gracias presidenta señorías vamos a tomar la palabra

hoy parece que vamos a tener la oportunidad de que se atienda al parlamento vasco en la defensa del derecho a la salud

si lo que escuchamos ayer al vecino de esta ciudad exalcalde de vitoria gasteiz

estamos convencidos de que se retirará la orden de octubre por la que se excluye de la cartera común básica de servicios asistenciales del servicio nacional de salud a determinadas mujeres del derecho a decidir su maternidad y contar para ello con la asistencia pública porque de eso estamos hablando

y de que no haya discriminación en función de criterios arbitrarios sobre la interpretación que un partido determinado tiene

por eso esta iniciativa registrada hace un año adquiere ahora plena actualidad más desde que el treinta y uno de octubre

se tradujo en realidad en la orden del treinta y uno de octubre que actualiza la cartera común básica de servicios asistenciales del sistema nacional de salud

entre mi grupo parlamentario el grupo nacionalista y el grupo eh bildu en julio del pasado año quien ha sido ministra hasta anteayer generaba

pero compartimos esa alarma con miles de personas que aun no siendo de nuestra ideología no entiende que se excluya de la prestación de servicios sanitarios a quienes optan por modelos familiares distintos al matrimonio entre hombre y mujer

el mismo gobierno que tan preocupado ha estado porque las mujeres no decidan libremente interrumpir su embarazo por no responder una decisión libre de maternidad el mismo

de que el descenso de la natalidad es un factor que va a afectar al futuro de las pensiones ese gobierno el gobierno de españa pone coto a que las mujeres puedan ser madres si esta contradicción de discurso genera ya una injusticia de base para aquellas mujeres que deciden no casarse

la iniciativa del gobierno de españa confirma la falta de convicción sobre lo que es el reconocimiento del sistema público sanitario en este caso en lo que se refiere a la prestación de asistencia para la reproducción asistida el gobierno del partido popular

de no creer en las mujeres de no apostar por la igualdad y ocultar a las mujeres y su papel en la sociedad y en la política

el balance de igualdad es muy negativo habiendo sido los años

tenemos un ejecutivo que ha estado trabajando sistemáticamente contra los derechos de las mujeres un gobierno que se ocupa solo

porque es evidente que los españoles y las españolas son ahora más pobres que hace tres años los salarios son más bajos y contamos

socioeducativos y sanitarios habiendo crecido solo las desigualdades reflejo todo ello de quién gobierna para un sector de los ciudadanos y no para todos

el partido popular ha dado claras muestras durante toda la legislatura de anteponer su ideología conservadora a los derechos y libertades de las mujeres hemos tenido unos cuantos ejemplos de ello en la afortunadamente aparcada ya reforma del aborto el exministro gallardón puso de manifiesto su prisa por eliminar la libertad de las mujeres a decidir sobre su vida alentando posiciones ultraconservadoras y la conflictividad y protesta social

a este intento de quitar a las mujeres la capacidad de decidir sobre su vida y de eliminar nuestro estatuto de ciudadanas de pleno derecho y así como a que

con esta reforma la vida y la salud de las mujeres de este país otro ejemplo es la negativa a finales del dos mil trece en el parlamento europeo a sacar adelante un informe

que los servicios de fertilidad y opciones reproductivas no sean discriminatorias

que son víctimas de violaciones así como aquellas mujeres cuya salud pudiera sufrir un riesgo grave este informe el de la eurodiputada socialista portuguesa edith estrela que también pedía que las mujeres

no sean perseguidas por la justicia no llegó ni siquiera a votarse porque por solo siete votos de diferencia salió adelante una resolución contraria

conservadores y reformistas así los populares españoles en la eurocámara

hicieron gala de su más profundo desprecio a las libertades de las mujeres y contribuyeron con su voto unánime a dar otro hachazo a nuestros derechos es en este contexto como llegamos a la iniciativa que debatimos hoy porque es otro ejemplo de atentado contra la igualdad de trato

los nuevos requisitos para los tratamientos públicos de reproducción asistida demuestran que el gobierno está empeñado en discriminar a todas las mujeres que deciden ser madres sin pareja y a las parejas de lesbianas que deciden

una vez más el pp utiliza la crisis para imponer su ideología

impidiéndoles el derecho a la maternidad esto se plasmó en la propuesta del ministerio de sanidad con las comunidades autónomas y que sigue dejando fuera claramente a las lesbianas y a las mujeres solas del derecho a la reproducción asistida propuesta pone de manifiesto la actitud homófoba y sexista del pp contraria a la diversidad familiar

de las personas y las familias la obligación de un gobierno tiene que ser muy diferente tiene que actuar protegiendo a todas las familias y apoyar la maternidad

una política que suponga una clara involución respecto a lo aprobado por el gobierno de zapatero en materia de reproducción asistida el estado de derecho tiene que garantizar a la ciudadanía en igualdad y un ejecutivo tiene la obligación de garantizar el acceso a la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos y no puede

marcar diferencias por razones de orientación sexual en el acceso a esos mismos derechos pero a quién pretenden engañar con esta medida discriminatoria

y una vez más imponerlo a toda la sociedad quieren fomentar la natalidad pero siempre y cuando

cambian radicalmente el discurso también conlleva una segunda discriminación pues porque excluyéndolo del sistema público aquellas mujeres lesbianas o solas

podrán acudir a clínicas privadas es decir de nuevo al igual que ocurría con la reforma del aborto el derecho de la reproducción asistida solo para el que se lo pueda pagar quien pueda pagarse el tratamiento podrá tener a sus hijos y nadie le preguntará qué orientación sexual tiene

si aquellas mujeres pueden pagárselo y podrán ser madres

la eliminación de dicho derecho para las parejas de lesbianas y mujeres solas que no puedan pagarse en una clínica privada ese derecho y por tanto

en la línea de privatizaciones que ha venido defendiendo el ministerio de sanidad asuntos sociales igualdad y una evidencia de cómo se entiende desde el gobierno de españa el acceso al servicio nacional de salud y a la sanidad universal y esta propuesta supondría además claramente una discriminación para las mujeres sin pareja

de la constitución española que señala que nadie puede ser discriminado por una serie de razones entre las que indica

según la organización mundial de la salud la salud incluye

a través del sistema de reproducción asistida en las mismas condiciones que lo pueden ser otras personas

médico y hay que facilitarles el acceso pero no si se trata de una pareja de dos mujeres o una mujer sola en este caso se considera

de la sanidad pública por qué el partido popular en vez de ampliar y mejorar las prestaciones públicas las ha recortado pero aprovecha estos recortes para imponer además un modelo social tradicional

en el año dos mil seis cuando se modificó la cartera de servicios se hizo de forma consensuada con las comunidades autónomas y con el principal partido de la oposición

sin embargo no ha buscado el consenso y ha reducido utilizando su mayoría absoluta unilateralmente la cartera de servicios por eso y dado que tenemos facultades de garantizar el acceso en igualdad

es fundamental que sigamos aplicando como hasta ahora políticas que permitan el acceso en igualdad a este derecho a todos los ciudadanos con independencia del tipo

porque estas mujeres tienen el mismo derecho a ser madres

exactamente el mismo en nuestras manos está

un buen sistema de salud universal equitativo e igual para todos los ciudadanos sin discriminaciones por condición personal o por su orientación

autónoma por eso defiendo la enmienda transaccional acordado hoy mi grupo el grupo socialista con el grupo nacionalista vasco y con el grupo eh bildu porque a través de él se señala

se reitera en el rechazo a cualquier tipo de discriminación y muestra su repulsa ante la concreta e injustificada discriminación por razón de sexo y orientación sexual

de octubre del dos mil catorce que actualiza la cartera común básica de servicios asistenciales del sistema nacional de salud y en este sentido este parlamento vasco

de acceso a tratamientos reproductivos de reproducción asistida de las parejas conformadas por dos mujeres así como por mujeres solas por entender que supone un grave quebrantamiento del principio de igualdad en el acceso a las prestaciones públicas sanitarias y por otro lado también el parlamento insta al gobierno español a cesar en cualquier tipo de discriminación

de remoción de los obstáculos que impidan la constitución de igualdad a las que están obligadas

a que deje sin efecto la orden a la cual he hecho mención y que concreta y actualiza la cartera común básica de servicios asistenciales del

así como al gobierno vasco a seguir manteniendo su criterio contrario al mismo y por otro lado ratifica la decisión adoptada por el gobierno vasco de preservar el derecho de acceso de los tratamientos de fertilidad de las mujeres sin pareja

con el resto de la población y en este sentido insta al departamento de salud a que siga prestando este servicio en las mismas condiciones de equidad e igualdad en la actualidad y por supuesto dar traslado de este acuerdo a la presidencia del gobierno al ministerio de sanidad a las cortes generales y así como a los departamentos de salud de

del consejo interterritorial de sanidad y quiero terminar siendo optimista porque como decía al principio parece que

y que quiere escuchar más y yo le propongo que comience escuchando a este parlamento

que no les pregunte qué estado civil tiene o cuál es su orientación sexual

cuál es su voluntad y ampare sus derechos y doy las gracias por el esfuerzo realizado a todos los grupos para llegar a esta enmienda transaccional nada más

argi adierazi zuen la falta de varón no es problema médico la falta de varón

har dezan familia nuklear heterosexuala katoliko apostolikoa creyente y obediente mujeres que se casan y son sumisas

sí gracias presidenta buenas tardes españa es uno de los países europeos que más ha recortado su gasto en sanidad entre dos mil nueve

y digo entre dos mil nueve y dos mil doce según un informe conjunto elaborado

y publicado ayer mismo en esos años el gasto sanitario en términos reales en la mitad de los países de la unión europea lo peor de este análisis a nivel general es la cierta tendencia europea a poner fin universal a la sanidad lo que está generando profundas desigualdades sociales grecia y bulgaria son los países más afectados el gobierno español en dos mil doce la ley de sanidad que consagraba este derecho como universal pasando a ser un derecho de los asegurados hoy

y criticamos otro más de los recortes sanitarios del gobierno de rajoy que se añade a una larga lista de

el pago de gran parte de las prótesis ambulatorias el copago la falta de asistencia para indocumentados la necesidad de acreditar por parte de los mayores de veintiséis años su falta de ingresos la reducción de las plantillas unida al empeoramiento de sus condiciones laborales o la reticencia al menos en un principio al suministro generalizado del medicamento para la hepatitis cien relacionados con el precio del medicamento esta medida de la que hoy hablamos la exclusión del acceso a tratamientos de reproducción asistida de las parejas conformadas por dos mujeres así como a mujeres sin pareja es además otra intervención del gobierno de rajoy para tratar de orientar a la sociedad en su conjunto hacia el modelo de familia que ellos consideran deseable

es otra intromisión religiosa sobre un estado laico como ya sucedió con su tentativa de modificar la ley del aborto que por suerte cayó por su propio peso es decir estamos ante la imposición de una determinada al conjunto de la sociedad y esto es inaceptable si consideramos que vivimos en un estado laico aunque por parte de la ya

ana mato se afirmó que no existía ninguna motivación de tipo ideológico en fin esto parece más que evidente por tanto nos encontramos

que mezcla recorte social recorte de derechos e imposición de una determinada ideología en concreto como decía antes imposición de una determinada moral al conjunto de la sociedad el hecho de regular quién puede o no puede tener hijos no es más que otro burdo intento por tratar de diseñar un modelo de familia ideal entre comillas desde una perspectiva

concreta el sistema de salud debe garantizar la atención del derecho a la reproducción de aquellas personas que lo soliciten por razones clínicas justificadas

la orientación sexual o el estado civil no pueden ni deben ser causa de discriminación o desigualdad de trato en el ejercicio del derecho a la reproducción

aprobada a los once meses de haber sido legalizado el matrimonio homosexual

la ex ministra de sanidad afirmó ya hace más de un año que la medida a aplicar no modificaba el decreto de dos mil seis en el que se establecía que la reproducción asistida únicamente se financiaba de forma pública cuando hubiera un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida sin embargo con la modificación definitiva de la nueva cartera básica del sistema nacional de salud

la indicación clínica establecida por la cual accedían a la reproducción asistida las mujeres solas y las lesbianas al convertirse la esterilidad en un

ana mato cualquier mujer que tenga un problema para tener un hijo apreciado por un médico tendrá acceso a la financiación pública de la reproducción asistida por tanto

quien decida sin embargo ella misma afirmó que no creía que la falta de varón sea un criterio médico

quedaban excluidas en opinión por lo tanto de este grupo

de trato y la no discriminación el derecho a la reproducción asistida no puede restringirse a las parejas conformadas por un hombre y una mujer por lo tanto me reitero en lo dicho y en lo que se ha dicho en que el sistema nacional de salud debe garantizar la atención del derecho a la reproducción de aquellas personas que lo soliciten por razones clínicas justificadas incluyendo a las parejas lesbianas y a las mujeres

la orientación sexual o el estado civil no pueden ni deben ser una causa de discriminación o desigualdad de trato en el ejercicio del derecho a la reproducción asistida no se puede restringir ese derecho o condicionarlo

clásica o tradicional formada por un hombre y una mujer no se puede incurrir

ni en más recortes sociales ni en más recortes de derechos por lo tanto y por todo ello votaré a favor de la transaccional que el resto de grupos han firmado

ofreciendo la posibilidad de tratamientos de fertilidad a mujeres estériles y también a mujeres fértiles

se hicieron públicas por esas fechas tanto en medios de comunicación como redes sociales o a través de diferentes asociaciones y colectivos

la noticia confirmando la continuidad de la prestación en euskadi

nosotros vamos a seguir ofreciendo esta prestación a las mujeres vascas creemos en un sistema sanitario público universal y de calidad que defiende la equidad de las personas y no estamos dispuestos a dar pasos atrás

no van a ser en base a una opción sexual o a un concepto restringido de unidad familiar sino en base a criterios exclusivamente éticos

y la noticia también recogía la opinión de upyd en palabras del señor maneiro abogaba por un sistema sanitario sin discriminación de ningún tipo

a que siguieran los pasos de euskadi por lo que no nos extraña el apoyo del señor maneiro a la hora de dar su voto afirmativo a la enmienda transaccional algo que le agradezco de verdad

que que no se puede discriminar en el acceso a estos tratamientos a personas por su orientación sexual

esta claramente aceptada la diversidad de las familias que puede abarcar desde las tradicionales hombre y mujer

mil treinta de dos mil seis de quince de septiembre se establece

actualización y regula en sus anexos el contenido de cada una de las carteras de servicios de la salud pública atención primaria atención especializada atención urgencias y demás

señalan que la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud

orden del ministerio previo acuerdo del consejo interterritorial del sistema nacional de salud el real decreto ley dieciséis barra dos mil doce de veinte abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad

supuso como todos ustedes saben un cambio sustancial en la cartera común de servicios del sistema nacional de salud al modificar el artículo ocho de la ley dieciséis barra dos mil tres de veintiocho de mayo diferenciando una cartera básica de servicios asistenciales una cartera común suplementaria y una cartera común de servicios accesorios en el consejo

para desarrollar la cartera básica de servicios del sistema nacional de salud

las prestaciones cuyo contenido sería preciso detallar clarificar y concretar este grupo de trabajo y repito fue un grupo de trabajo técnico constituido por científicos

las actividades para detectar las enfermedades en fase presintomática mediante cribado la genética y la reproducción humana asistida

y para su abordaje se crearon grupos de trabajo de expertos como señalaba para detallar y actualizar dicho apartado de la cartera de servicios

lo que corresponde al abordaje de la reproducción humana asistida se ha realizado mediante grupos de expertos constituidos por profesionales designados por las comunidades autónomas y el ministerio

de la red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones del sistema nacional de salud

en base a la evidencia científica disponible eso es lo que se ha hecho señorías grupo técnico en base a la evidencia científica disponible el objetivo del grupo

asistenciales y a la vez permitiendo homogeneizar y optimizar las prestaciones

con los gobiernos del partido socialista y con las diferentes ministras del partido socialista y eso es lo que ha hecho este gobierno

optimizar las prestaciones en este ámbito para todo el sistema nacional de salud con el fin de evitar inequidades entre comunidades autónomas

y dependiera de dónde uno viviera o no o sabía cuestiones tan básicas que uno tenía cubiertas o que no tenía cubiertas

el grupo acordó una propuesta de criterios a tener en cuenta para entrar en un programa de reproducción humana asistida así como las condiciones para acceder a cada una de las técnicas esto fue lo que especificó y lo que concluyó este grupo de trabajo

se ofertan dentro del sistema nacional de salud con un fin terapéutico ante situaciones en las que existe una patología

o con un fin preventivo para evitar la transmisión de enfermedades graves este fue el criterio de este grupo de científicos y por lo tanto lo que se ha recogido posteriormente en la orden

del real decreto dos mil seis que el partido socialista ni se molestó en detallar de quince de septiembre no se excluye de forma expresa a parejas

aquí y si no les insto a cualquiera de ustedes a que me digan la frase exacta donde se hace esa afirmación en esta orden como decía se concreta y actualiza la cartera común

a la reproducción humana asistida en dicha norma

para prevenir la transmisión de enfermedades o trastornos de base genética o de otro origen graves de aparición precoz

y postnatal y que sean evitables mediante la aplicación de estas técnicas en determinadas situaciones especiales eso es lo que aparece señorías en esa orden

y específicos para cada una de las técnicas que se detallan en esta cuestión

se ha dado un paso importante en la homogeneización de esta prestación porque antes no había criterios de homogeneización en esta prestación a pesar de que al partido socialista se le llenaba la boca con sus sucesivas ministras al hablar de homogeneización

nada de nada además las comunidades autónomas y mutualidades han de facilitar obligatoriamente las prestaciones recogidas en la cartera común de servicios del sistema nacional de salud entre las que se encuentra la reproducción humana asistida por lo cual se ha de garantizar el acceso a esta prestación a las personas de su ámbito de competencias

sin perjuicio de que puedan añadir prestaciones complementarias a dicha cartera

pueden establecer prestaciones complementarias a esa cartera común básica que se ha establecido y por lo tanto se ha clarificado que desde el dos mil seis

el citado decreto se estaba sin desarrollar en modo alguno

presentado en el consejo interterritorial fue la base para realizar

que concreta la cartera básica de servicios del sistema nacional de salud cuya finalidad es la de garantizar la equidad en el acceso a los usuarios en el sistema nacional

que propuestas por los profesionales y sus sociedades científicas

eficiencia efectividad seguridad y utilidad terapéuticas así como las ventajas y alternativas asistenciales

decretos que he señalado en mi intervención son las personas que cumplen los criterios clínicos establecidos

asistenciales del sistema nacional de salud sin ninguna excepción por criterios de orientación sexual o tipología de relación afectiva y si no les vuelvo a instar otra vez a que me digan la frase exacta en donde se produce esa exclusión o mención a un colectivo se habla de personas el real decreto del dos mil seis decía que se atenderá a las mujeres y a los hombres infértiles bajo criterios de implicación clínica con un diagnóstico concreto eso es lo que se ha respetado y lo que no se desarrolló además que es lo que ha hecho este gobierno que es desarrollar la previsión contenida en el decreto

me llama la atención que el partido socialista una vez más utilice un tema para hacer demagogia y para hablar con rigor y yo lamentablemente también

que no haya sido la señora roncal firmante de la iniciativa la que llevaba esta iniciativa porque quizá los criterios defendidos desde esta tribuna hubieran sido otros porque creo que algo entiende en la materia y desde luego no se hubiera la demagogia barata que ha hecho la señora sánchez en esta

y mire señora sánchez cuando hablamos de despilfarro yo creo que ustedes deberían de recordar las cifras que dejaron de deuda sanitaria

eso es lo que dejaron ustedes y este gobierno a través de un decreto y con medidas concretas lo que ha hecho es arreglar el

ustedes en las cuentas públicas entre ellas en el sistema nacional de salud no hay nada más en contra de la equidad de la solidaridad de la igualdad que lo que hicieron ustedes un agujero en las cuentas

sistema nacional de salud esto es lo que ha hecho el gobierno y como se me va a acabando el tiempo sí que tengo alguna cuestión pero lo señalaré en la réplica hombre

se ha inventado de homogeneizar y concretar todo lo relativo a la fecundación humana asistida y por lo tanto claridad en búsqueda de equidad de homogeneizar criterios que no fue capaz de hacer

papelón que le ha tocado hacer hoy en este parlamento en la iniciativa que estamos debatiendo pero nosotros los diferentes grupos hemos centrado este tema en donde hay que centrarlo que es en el tema de la igualdad y no en el tema

que entienda más de igualdad pues también a lo mejor hubiera entendido más lo que hemos dicho los demás en este tema lo mejor que pueden hacer desde luego
es modificar la orden del treinta y uno de octubre del dos mil catorce beno isiltasuna isiltasuna

siempre ha sido un ejemplo a seguir en materia de reproducción asistida y tenemos que intentar seguir siéndolo y yo creo que vamos en la misma línea ustedes desde el partido popular pueden pintar como quieran lo que han recogido dentro de la orden de treinta y uno de octubre han podido intentar homogeneizar la cartera de servicios pero desde luego lo que han conseguido es un atentado a la igualdad de derechos de las parejas conformadas por dos mujeres o mujeres solas porque lo que sí es evidente es que cuando se está pidiendo un diagnóstico previo se está excluyendo de ese derecho a esas

de mujeres fértiles y no van a tener ninguna posibilidad

de acceder dentro del sistema público de salud al mismo salvo que lógicamente como ya he dicho antes aquellas que tengan medios suficientes puedan irse a las clínicas privadas y como siempre ustedes que se vayan

y ahí se tienen los derechos pero del sistema público se van recortando los derechos y es sistema y la sanidad universal para ustedes tiene otro concepto

yo vengo a defender aquí y no me quiero extender más porque yo creo

grupos políticos ha quedado perfectamente clara cuál es la situación

la enmienda transaccional también es muy clara y yo desde luego quiero dar las gracias a todos los grupos que hemos hecho un esfuerzo por

esta enmienda transaccional aunque hayamos dejado algunos puntos unos y otros para llegar

tiene especial importancia lo que acordamos hoy aquí porque en el fondo está la defensa de la igualdad de los derechos de todas las personas y ante esa defensa de la igualdad estoy satisfecha que se haya producido igual que se produjo en el caso

una unión de todos los partidos políticos para defender el derecho a la igualdad de esas mujeres que tienen perfecto derecho como una pareja heterosexual a la maternidad si efectivamente

y quieren tener sus hijos muchas gracias y también agradezco al parlamentario de upyd porque aunque no ha firmado esta enmienda transaccional ha manifestado públicamente ya en esta

esta enmienda porque yo creo que además merece la pena que todos vayamos juntos en la defensa de derechos importantes y en la defensa de la igualdad de derechos

bestalde señora garrido usted nos dice que se trata únicamente de una orden que pretende homogeneizar el sistema tan correcta y necesaria pero es que está cargada de intencionalidad esa orden una intencionalidad política e ideológica y a este gobierno al gobierno vasco no le gusta la homogeneidad

siempre por supuesto desde el respeto a las instituciones y sus competencias y el respeto a los derechos y libertades de las personas y por eso mismo este gobierno sigue garantizando el derecho al acceso a los tratamientos de fertilidad delas mujeres sin pareja o con pareja del mismo sexo en pie de igualdad con el resto de la población en euskadi

un tema y además repito la iniciativa no la firmaba usted la firmaba otra compañera de su grupo que no pasa nada que no pasa nada pero bueno los criterios desde luego han sido absolutamente distintos y lo que ha enfocado

recurre a la descalificación y desde luego eso es bastante lamentable pero mire hablando de
lo que ha hecho este gobierno mesedez isiltasuna hitz egiten ari dela

del partido popular y me he referido a las ministras de sanidad del partido socialista porque es que han sido ministras creo si no recuerdo

ministras con el gobierno del señor zapatero

pero fueron incapaces de hacer un calendario vacunal único eso es trabajar en favor de la equidad mire en el ámbito de los tratamientos del diagnóstico implantacional la posibilidad de que tienen los padres de elegir

para evitar que los niños tengan enfermedades
eso se aprobó con el apoyo del partido popular isiltasuna mesedez en la ley de investigación biomédica pero el partido socialista fue

este gobierno con el acuerdo unánime de todas las comunidades autónomas los que han decidido y aquí el señor consejero que sabe muy bien de lo que hablo incluirlo

de la ley de investigación biomédica a la cartera de servicios ha sido también este gobierno por lo tanto el que ha incluido ese diagnóstico implantacional también se ha aprobado por unanimidad el lavado seminal que ustedes fueron por ponerle unos ejemplos cuando me hablaba de despilfarro ya le he dicho

y como dejaron la situación sin pagar a los proveedores farmacéuticos

en deuda por no hablar del despilfarro en los medicamentos

absolutamente necesarios por lo tanto lecciones en este tema las justas porque ustedes dejaron y ha tenido que venir un gobierno no solo en las distintas áreas sino concretamente

adoptar medidas para garantizar precisamente la sostenibilidad del sistema y mire cuando me habla de ir a las clínicas privadas

ha planteado en esta cámara por ejemplo reducir en el programa de detección precoz del cáncer de mama

hay muchas mujeres que van a las clínicas privadas porque el programa aquí comienza a partir de los

quiero decir que apelar a ciertas cuestiones cuando es un argumento también que vale para otras cuestiones y ustedes no lo dan por válido pues la verdad evidencia una falta muy pobre de argumentos que es lo que usted ha manifestado hoy en esta

señora del partido nacionalista vasco me parece muy bien que euskadi pueda complementar determinados

de servicios está muy bien y si tiene el señor consejero dinero y el departamento dinero pues que complemente pero yo también me preocuparía por los hospitales porque recientemente hemos conocido

y para llegar al siguiente creo que hay que llegar al número cincuenta y siete que es el de basurto por lo tanto está muy bien que haya dinero pero sobre todo también tiene que haber dinero para las infraestructuras hospitalarias y en ese sentido

desde el grupo popular nos vemos obligados a presentar nuevamente ante esta cámara esta iniciativa referente

en el territorio histórico de álava para el año dos mil doce y que a día de hoy no se han ejecutado

tienen por un lado en cumplimiento de la directiva marco del agua y por otro

y aplicar la normativa correspondiente en el tratamiento de aguas residuales ambas instituciones vieron la necesidad de afrontar la ejecución de una serie de infraestructuras hidráulicas

firman un primer acuerdo para la ejecución y financiación de una serie de obras

en el año dos mil siete en la mesa de seguimiento de este acuerdo se pone de manifiesto el desfase de ejecución de lo comprometido

está en el inicio de alguno de los proyectos comprometidos como decía en la mesa de seguimiento de este acuerdo

algunos proyectos así como la necesidad de abordar otros nuevos como consecuencia de estas nuevas valoraciones se ve la necesidad de firmar

las modificadas y las pendientes de ejecutar todo ello da lugar a un nuevo convenio que se firma en el año dos mil ocho con un presupuesto de casi setenta y cuatro millónes de euros cincuenta por ciento para cada institución periodo de ejecución dos mil ocho dos mil doce

que hay una persona hablando un parlamentario hablando y no puede ni mesedez bai ezta sí gracias señora presidenta

todo ello da lugar a un nuevo convenio que se firma en el año dos mil ocho con un presupuesto de casi setenta y cuatro millónes de euros cincuenta por ciento para cada institución periodo de ejecución dos mil ocho dos mil doce la realidad es que a día de hoy una gran parte de estas obras están pendientes de ejecutar como pueden comprobar en algunas de las respuestas que hemos solicitado al gobierno y que

lo decíamos en el año dos mil diez en un debate muy similar la situación económica ha variado sustancialmente desde el año dos mil cuatro al día de hoy pero también es verdad

también para las instituciones para todas tanto para el gobierno vasco como para la diputación foral de álava sin embargo

y el gobierno vasco no llega al veinte por ciento de ejecución de lo comprometido y convenido estos son datos objetivos desde el grupo popular hemos presentado la iniciativa que ustedes conocen y hemos llegado a una enmienda de transacción con los grupos que han presentado enmienda que han sido grupo socialista

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a elaborar en el plazo de tres meses un informe explicativo de las causas por las que no se han ejecutado las obras previstas

suscritos entre la diputación foral de álava y el gobierno vasco

programen un calendario de ejecución de las obras previstas en los acuerdos marco anteriormente citados y efectúen una planificación económica de las obras pendientes y tercero el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que presente en la comisión de medioambiente y política territorial un calendario de ejecución de obras

este tercer punto que no estaba recogido en la iniciativa original lo que pedimos al gobierno es que

durante el año dos mil doce dos mil trece y dos mil catorce hay obras que corresponden al gobierno vasco

exacto conocimiento de cuáles son y cuáles son los plazos de ejecución porque efectivamente de ellos se derivará

es tener una relación y conocimiento exacto de cuál es el compromiso pendiente de este gobierno y para ello necesitamos

explicativo por lo tanto esto es lo que vamos a poner a votación nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

únicamente para decir que votaremos a favor de la enmienda transaccional que hemos firmado está claro quedesde las diferentes instituciones afectadas se han ido firmando convenios sucesivos desde un diagnóstico compartido y que hay muchas obras hidráulicas que son infraestructuras hidráulicas necesarias para solventar los problemas de la provincia de álava y lo único que esperamos es que después de unanimidad en el parlamento y todas las fuerzas políticas afectadas por fin se cumplan y el gobierno sobre todo que es quien más
había dejado de cumplir el compromiso adquirido se ponga a hacer lo que debe de hacer nada más eskerrik asko rojo

iba a rociar a los demás o se lo iba a tirar por la cabeza

señora lópez de ocariz la verdad es que de usted no se puede decir que no sea

el del cumplimiento del gobierno vasco de los compromisos adquiridos en

y en ese sentido hemos coincidido en la pasada legislatura en su objetivo apoyamos en el dos mil diez

hoy únicamente dos cuestiones por parte de nuestro grupo una de ellas es

cuando las partes lo firman pueden compeler a su ejecución inclusive ante los tribunales y este no es el caso estos son acuerdos marco que están sometidos a la existencia de disponibilidad presupuestaria y bueno centrándonos ya en el asunto este de la disponibilidad presupuestaria en este caso

la conspicua de la causa de no existencia de crédito como decía

pero habrá otras causas y una de ellas es la que desde luego está ligada con un punto que hemos introducido en la medida transaccional que es la relativa a la inclusión de los

es que las actuaciones deben estar incluidas en la planificación hidrológica con participación pública

no cumplían ese requisito y la segunda cuestión es que

de la recuperación de los costos económicos y no solamente el mantenimiento digamos la financiación de lo construido sino el mantenimiento posterior por ejemplo habrá que plantearse el tema del coste de lo que el ciudadano va a pagar por metro cúbico de agua que consume

y que ya ligo este asunto con la otra cuestión que decía el señor maeztu qué es lo que ocurre con la estación depuradora de aguas residuales de agurain que precisamente porque

o de órganos encargados de la gestión del mismo con capacidad técnica y económica no existe y por tanto el gobierno

eso comprometido por tanto como digo lo importante es alcanzar esos acuerdos seguir trabajando discutiendo

y esperar a la respuesta del gobierno y los planteamientos que nos va a hacer con el compromiso que hemos adquirido aquí en esta cámara eskerrik asko eskerrik asko